para qué somos parlamentarios y parlamentarias y para qué celebramos

porque solo si empezamos respondiendo a las mismas podemos abordar de verdad el fondo de este debate porque hay quienes quieren plantear esta cuestión

la finalidad de la fiscalidad quienes quieren que renunciemos a nuestra responsabilidad política que no es otra que la de dar respuesta a los problemas que los ciudadanos nos demandan y de hecho podíamos venir a esta cámara a decir a los ciudadanos

tenemos que introducir nuevas medidas de repago sanitario podíamos venir a decir a los ciudadanos que como no recaudamos lo suficiente

o incrementar las tasas académicas podíamos venir a decir que como los ingresos han disminuido tenemos que prescindir de nuestra apuesta por la innovación y la investigación

a lamentar ante los ciudadanos que a falta de financiación suficiente eliminamos las ayudas de protección social podíamos venir a exponer ante los empresarios

y que lo mismo que los bancos no les financian las instituciones tampoco les vamos a ayudar todo esto se puede hacer de hecho está ocurriendo exactamente así en un entorno bien próximo e incluso algo de eso había

en esta cámara lo que hoy hacemos es un ejercicio exactamente en el sentido contrario venimos a esta cámara a decir a los ciudadanos que sus representantes vamos a explorar todas las vías para encontrar nuevos recursos

para poner esos recursos al servicio de la sanidad de la educación de la protección social de la investigación y del respaldo a las actividades productivas venimos

porque sabemos también a qué queremos destinarlos venimos a analizar cómo mejorar la recaudación para destinar recursos a un tejido productivo

gasolina económica y al conjunto de los ciudadanos con igualdad de oportunidades a través de unos servicios públicos esenciales venimos a hacer un debate de país del país que queremos de cómo queremos financiarlo y de cómo repartimos entre todos los esfuerzos para conseguirlo

en este pleno es el camino opuesto al de la resignación es el camino de la acción y de la utilidad de la política

de tendremos el estado de bienestar que nos podamos pagar

los representantes de los ciudadanos de euskadi vamos a darle la vuelta a ese eslogan para decidir cómo queremos pagar el estado de bienestar que queremos y que necesitamos y es imprescindible que todos aquí

desde luego los socialistas lo tenemos y a nadie puede extrañar ni nuestra actitud ni nuestras propuestas esta es la tercera ocasión en poco más de un año

políticas de crecimiento económico y sostenimiento de servicios públicos tres ocasiones propiciadas todas ellas por el partido socialista en el gobierno y en la oposición porque esta discusión era entonces tan pertinente como lo es ahora y llegar a unos criterios compartidos es imprescindible lo era antes

y que sea este parlamento donde se fijen esos criterios compartidos es necesario también lo era antes y lo es ahora el ejercicio que hoy nos comprometemos a hacer

una visión sobre la reforma fiscal una forma de entender la recaudación de impuestos con criterios de equidad de progresividad de justicia de eficiencia y suficiencia y sobre esos criterios incorporar las propuestas que todos podamos realizar y todo con un fin muy concreto la fiscalidad tiene que ser un instrumento útil

que permitan a los ciudadanos que son quienes pagan los impuestos contar con los servicios públicos que reclaman y con el apoyo para emprender sus proyectos personales empresariales

no deja de sorprendernos que algunos hayan azuzado una especie de campaña del miedo sobre esta reforma que hoy empieza su recorrido y que continuará en las juntas generales campaña que se desmonta con los datos reales de las propuestas fiscales y desde luego resiste cualquier comparación con nuestro entorno más cercano

o bajadas de impuestos nosotros no hemos venido a eso en euskadi por diferentes circunstancias hemos obviado durante muchos años demasiados años

en los años ochenta comenzábamos a levantar el proyecto común de euskadi también el de la fiscalidad fuimos adoptando medidas fiscales incentivos deducciones desgravaciones diferentes figuras que se han ido retocando de forma parcial desde entonces en apariencia el sistema funcionaba incluso en las distintas haciendas presumían de superar con creces

y de repente una crisis nos estalló en la cara sin entrar en sus motivos el sistema económico se colapsó en euskadi es verdad que el proceso de crisis comenzó más suave y eso hizo que viviéramos una especie de espejismo

no fuera con los vascos y por eso podíamos vivir con el mismo modelo fiscal que en épocas de bonanza pero en un par de años nuestra recaudación se situó

dos mil cinco pero con más gastos abordábamos así una crisis con el mismo modelo fiscal que en época de crecimiento con esa compleja tela de araña

y más excepciones y eso hacía necesario una reflexión profunda

los socialistas teníamos ya claro el país que queríamos el moderno sostenible solidario y competitivo

no fue posible no voy a repasar primero el silencio

a esa idea cada cual deberá reflexionar sobre las consecuencias que aquella actitud ha podido tener en la vida de muchos ciudadanos vascos y de muchas empresas pero nosotros nos cejamos y allí donde sí ha habido receptividad hemos seguido trabajando en esa línea

decidir sobre los ingresos para poder decidir sobre los gastos

estos dos años es lo que impulsamos ahora para el conjunto de euskadi hemos considerado importante explicar para qué hacemos esta propuesta fiscal porque solo si se entiende el para qué es posible que debatamos de verdad el contenido

se han propiciado muchas informaciones que prescindían de lo objetivo para de forma sesgada sembrar miedo es curioso porque esto no ha ocurrido en los debates anteriores y tampoco se ha realizado esta crítica de forma generalizada

ni cuando rajoy emprendió y puso en marcha una subida tributaria a la totalidad

ahora cuando queremos hacer una propuesta compartida para el conjunto de euskadi que deja el esfuerzo tributario de los ciudadanos y de las empresas por debajo del territorio común contra lo que dicen algunos y que bajará también si se aprueban estas propuestas la factura fiscal a muchos guipuzcoanos

a alguno le han salido sarpullidos probablemente porque tocan sus bolsillos los que no se habían tocado hasta ahora

y dejar claro algunas cosas que pagarán muchos que no pagan a esos sí les va a subir la factura fiscal

y abuso de la ingeniería fiscal para adelgazar su contribución al sostenimiento de los servicios públicos

y quienes asuman herencias por encima de los cuatrocientos mil euros pagarán más quienes obtienen importantes rentas de capital

mucho menos que quienes solo dependen de sus nóminas esos son los que se van a haber afectados por esta propuesta de reforma fiscal

se inyectan de nuevo en el tejido productivo y en los servicios básicos y eso es exactamente lo contrario a ir contra el bolsillo de la mayoría

lo que va de verdad contra el bolsillo de la mayoría de los ciudadanos porque atenta contra su calidad de vida son los copagos sanitarios la disminución de las becas

los tajos sociales y las subidas generalizadas de tasas de matrículas o de billetes de transporte en nuestra propuesta fiscal planteamos que las rentas por trabajo las que tienen la inmensa mayoría de los vascos las que proceden de una nómina

y a partir de esa cantidad se establecen nuevos tramos que aumentan la progresividad los mismos por cierto que están en vigor en gipuzkoa podíamos haber ido más allá por supuesto en esas rentas altas y solo eso sí podíamos haber tomado como ejemplo

que sitúa tres puntos por encima esas tarifas fiscales y que incluso algunas autonomías como cataluña las amplían a siete puntos por encima podía haber sido así pero hemos considerado que el efecto era menor porque a partir de ciertas cantidades es más habitual tributar no a través de este impuesto sino a través del impuesto de sociedades al que luego me referiré y donde se ha actuado con otras iniciativas por tanto

de los vascos sí hay una subida del uno por ciento en la mayoría de las rentas procedentes de ahorro

en una rentabilidad de mil euros anuales para un depósito

en un depósito corriente el dos por ciento anual supone diez euros más y este no es un dato estadístico es una referencia la pregunta es

desde luego la inmensa mayoría no y por lo tanto deberán pagar menos incluso de esos diez euros de más y para que quede clara nuestra posición en este asunto los socialistas hemos planteado varias veces y hemos coincidido por cierto con gran parte de esta cámara

las rentas de trabajo y las de capital debería igualarse que debe llegar un momento

se sumen todos los ingresos y esa suma sea la cantidad sobre la que se apliquen los tipos impositivos porque de otra manera

a dos formas de obtener los ingresos y eso no es justo y esta dualidad que aún se mantiene en euskadi y también en el resto de españa es anacrónica apenas hay cuatro o cinco países europeos que mantienen este sistema

que existen amplísimos colectivos que hace décadas construyeron su futuro el complemento de sus pensiones con las rentas que les generaron los ahorros que habían podido hacer

en inmuebles que tienen alquilados etcétera no lo obviamos y por eso no exigimos en este caso ir más allá pero sí mantenemos esa reflexión para un futuro habrá que ir a la tributación por la suma de todos los ingresos del contribuyente sea cual sea su procedencia y en cuanto a los tipos en irpf no hay más no lo hay

las deducciones y las desgravaciones y aquí tengo que recordar que este parlamento ya se ha pronunciado al respecto sin ir más lejos en el último pleno monográfico de fiscalidad

eliminando todas aquellas que no fueran eficaces porque las deducciones

son figuras que se incluyen en los sistemas tributarios para lograr un fin concreto cuando se deduce por alquilar la vivienda figura que por cierto proponemos mantener no es para premiar al contribuyente ni para aliviar su carga fiscal

como solución de vivienda y porque incluir ese alquiler hace que afloren las rentas de alquiler por tanto por una parte se deduce al inquilino y por otra se recauda del arrendador si se deduce la rehabilitación

y si se deduce por compra de vivienda es porque en algún momento del pasado

la actividad inmobiliaria esa que ahora está tan denostada y tendremos que decir que esa fue una idea cuanto menos discutible

en toda españa la deducción por compra se trasladó al precio de los pisos

si se hubiera alentado más la rehabilitación y el alquiler y eso es algo en la que coinciden los expertos en el resto de españa de hecho esa deducción se ha eliminado totalmente los socialistas creemos que habría que repensar también para el futuro esta figura pero también entendemos que tenemos margen

con una previsión de alivio por la vía de la deducción no vean de repente paralizadas todas sus expectativas por eso no hemos eliminado la deducción de vivienda pero cada contribuyente dispone del mismo crédito fiscal treinta y seis mil euros

pero retrasamos eso sí ligeramente el tiempo en que puede hacerlo

los dividimos por los mil ochocientos que son como máximo hasta ahora deducibles

el contribuyente tardaría en caso de llegar al límite veinte años en agotar ese crédito con el nuevo límite tardará unos veintitrés pero en esto tampoco vamos a pasar por alto

así que mienten siento decirlo así pero así es mienten quienes dicen que eliminamos esta deducción o que ese cambio de límite va a provocar perjuicios

a amortizar la compra de una vivienda como si todo el mundo agotara el crédito fiscal del que dispone

aunque igual los que protestan son los que hacen trampas y lo tienen como bien deducible falseando que sea su residencia habitual el problema para pagar la vivienda no es precisamente la deducción es que hayas perdido tu puesto de trabajo y que no puedas pagar la hipoteca

por el que anualmente dejamos de recaudar entre cuatrocientos y quinientos millónes de euros proponemos simplemente que sea algo más limitado

impulsar medidas para generar empleo y que el ciudadano pueda afrontar el pago de su vivienda y el resto de sus necesidades

a planes de pensiones esta es una fórmula de ahorro para el futuro muy utilizada muy utilizada por quien puede ahorrar para el futuro dicho sea de paso

porque son aportaciones de ahorro no disponibles durante muchos años luego quien invierte ahí es porque ese dinero que invierte no lo necesita de forma inmediata si no se opta evidentemente por otras formas de ahorro pues bien aunque sea algo muy utilizado la capacidad de destinar seis mil euros anuales es decir unos quinientos euros mensuales

sobre la que pagar impuestos no está precisamente al alcance de la inmensa mayoría de ciudadanos a la que algunos apelan por esa vía se nos van cada año

sinceramente creemos que hay margen en esos mil millónes que dejan de pagar quienes tienen más capacidad de ahorro

a necesidades más urgentes para la sociedad y quien disponga de esa capacidad de ahorro las entidades financieras les ofrecen múltiples posibilidades aunque por ellas no se puedan deducir también ponemos límite a la deducción por edad es verdad porque no es justo que tener una edad u otra sea de por sí un criterio sin tener en cuenta las rentas y que alguien por razón de edad pueda deducirse una cantidad determinada aunque sus rentas sean superiores a la media

desde luego no responde a nuestro modelo no es justo que eminentes banqueros y empresarios de edad es verdad que de edad accedan a esa deducción

y hasta aquí lo referido a impuestos que afectan a la mayoría a la que algunos apelan con un añadido el impuesto de sucesiones hay quien efectivamente defiende

puesto que lo que se hereda ya ha pagado sus impuestos lo hemos oído aquí en esta cámara en varias ocasiones hay quien entiende por otra parte que eso es un nuevo ingreso que los contribuyentes heredan y que por lo tanto debe tener lógicamente una carga tributaria lo que proponemos es que se pague un mínimo por cada heredero

y eso significa que quien herede uno millón de euros pagará aproximadamente unos nueve mil quien herede medio millón

no son desde luego cantidades que se puedan calificar de tasa de expropiación de patrimonios familiares

en cuanto al impuesto de sociedades el que afecta a los beneficios de las empresas repito a los beneficios de las empresas no a la actividad económica de la misma hemos decidido empezar a poner orden no puede volver a ocurrir que grandes corporaciones con sede en nuestros territorios conocidas por todos ustedes

puedan desgravarse hasta el infinito y acabar teniendo una tasa real del cero por ciento no puede ser

una empresa que gane dinero debe pagar como mínimo un trece por ciento de sus beneficios

y exenciones esa especie de laberinto por el que el común de los ciudadanos y pequeñas empresas se pierden pero donde algunos saben encontrar un buen refugio para

al eje de la reforma tributaria donde más recursos podemos obtener y al que curiosamente quienes están azuzando ese discurso del miedo prestan muy poca atención es el compromiso con medidas concretas para atajar esa elusión fiscal a la que me acabo de referir y el de la ingeniería que permite reducir la factura con hacienda

de los que más tienen y más ganan y el compromiso con el fraude esa vía de escape a la que solo se le han puesto parches pero que necesita una reparación general

que por otra parte ya se habían acordado también en otros plenos de esta cámara y que los ciudadanos deben saber que vamos a poner en marcha la interconexión entre las distintas haciendas forales

que pretenden escapar de sus obligaciones también se va a poner en marcha una comisión de lucha contra el fraude que realice programas concretos de actuación vamos a conocer de forma periódica la evaluación de estas actuaciones para perfeccionarlo

y humanos para esta tarea hoy por ejemplo la probabilidad de que una empresa reciba la visita de un inspector viene a ser de un cero coma ocho por ciento

como buscar la colaboración activa de las empresas y seguro que hay que mejorar el sistema legal para que defraudadores sepan que no habrá impunidad para ese ejercicio de insolidaridad pero se ponen en marcha mecanismos inéditos en euskadi en esta tarea

donde además nos comprometemos a definir el destino concreto de esos nuevos recursos los que lleguen del fraude los que lleguen de la eliminación de deducciones y exenciones ineficaces los que lleguen de las rentas más altas para devolverlos a los ciudadanos mejorando los servicios que reciben y a las empresas con planes que les ayuden a financiarse a crecer y a crear empleo y ese y no otro es el sentido del debate que celebramos el de entender que la fiscalidad no es ni mucho menos un fin en sí mismo

progresiva y equitativa a las arcas públicas nos hace ser a todos partícipes de una sociedad que ofrezca igualdad de oportunidades para todos

y cada uno reciba en función de sus necesidades eso es todo lo que los socialistas hubiéramos podido conseguir pues no evidentemente no

que va a ser eficaz va a ser más justo y desde luego va a ser más útil para los ciudadanos y para eso hemos venido y para eso estamos en esta cámara muchas gracias

dispuestos hacer cesiones como creemos que el resto también tendrán que hacer porque el acuerdo requiere que todos que todas dejemos algún pelo en la gatera bilkura egunkaria

hamabostean egindakoa son las palabras con las que nuestro grupo parlamentario manifestando la rotunda voluntad de lograr un acuerdo entre partidos que dotara de estabilidad a euskadi

el debate de fiscalidad celebrado en este mismo parlamento hace siete meses y lo hemos logrado gaurko eztabaida honetan

euskal ongizate sistemaren jasangarritasuna bermatzeko hemos dado un importante y beneficioso paso que no nos ha desplazado ni un milímetro del vigente

este acuerdo respeta rigurosa y escrupulosamente las competencias que a cada institución le corresponden según el marco jurídico

el mismo papel que tenía anteriormente hemos modificado posturas no lo vamos a negar en absoluto porque

moverse para llegar a acuerdos más amplios por el bien de euskadi esa capacidad de negociación es a nuestro juicio un valor en sí mismo negoziatu gura denean

metodología partiendo del respeto riguroso

el parlamento vasco hoy como lo ha hecho en otras ocasiones debatirá y acordará distintas propuestas de resolución

los partidos políticos firmantes de este acuerdo también se han comprometido nos hemos comprometido a defender y apoyar

no es una cuestión de jerarquía institucional se trata de que dos partidos hemos acordado unos contenidos en materia fiscal que traemos aquí

para su debate y acuerdo con el resto de partidos aquí representados lo hemos traído al parlamento vasco y lo vamos a llevar a las juntas generales

en la confianza de que como en otros debates en este pleno nuestras propuestas logren el apoyo de más grupos parlamentarios

ateratako titular batzuk irakurriko ditut lópez se muestra dispuesto a tratar de pactar una reforma fiscal y el resto de la oposición lanza duros reproches al lehendakari

afirma que es difícil llegar a acuerdos cuando no hay nada

quiroga ha apuntado que esta fórmula de reuniones y de debates no es operativa y ha anunciado que el pp vasco

sus propuestas a partir de ahora en el parlamento vasco

creemos sinceramente que con algunas objeciones el resto de partidos bien podrían suscribir

en una parte importante de la misma también creo que son absolutamente conscientes de la urgente necesidad de abordar sin más dilación esta reforma en eaj nos gusta

hemos dialogado negociado y finalmente les proponemos esta reforma del sistema tributario avalada por dos partidos políticos

y tantas otras ocasiones en este parlamento se hacen propuestas una propuesta que consideramos es una buena solución para

de la grave situación que atravesamos también en euskadi

nacionalistas vascos terminamos con el mismo mensaje

hoy y con el que concluimos el anterior debate de fiscalidad nos hemos empleado

y créannos que nos emplearemos a fondo para lograr un consenso más amplio hemos estado dispuestos a hacer cesiones y así lo hemos hecho

también tendrán que hacerlo porque eso es la negociación ahalak eta ezinak egingo ditugu zerga sistemaren

muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos señor lehendakari consejeros tengo la sensación seguramente equivocada de que desde que upyd está en este parlamento en fin ustedes no hacen otra cosa que debatir sobre fiscalidad me da la sensación de que un solo parlamentario puede también tener cierta influencia o incluso mucha influencia

y también en el devenir de los debates parlamentarios de esta cámara no hace falta más que echar la vista hacia atrás para ver

de iniciativas parlamentarias planteadas por upyd en relación a la fiscalidad espero muy sinceramente que en el futuro y seguramente

upyd en ese asunto no solamente nos dediquemos a debatir sobre la fiscalidad sino que efectivamente y finalmente sea en este parlamento donde se decida la fiscalidad de los ciudadanos vascos esto es lo que nosotros hemos venido defendiendo y creo que esa idea

les duele mucho se va a ir abriendo paso y finalmente vamos a conseguir ese objetivo de que las competencias fiscales que a día de hoy residen

pasen a este parlamento para poder tener una sola política fiscal para el conjunto de los ciudadanos vascos y de esa forma defender la máxima igualdad de los ciudadanos esto en fin ha sido uno de los grandes objetivos de upyd y sigue estando encima de la mesa como decía al principio

hemos planteado muchos debates sobre la cuestión en fin ya en diciembre del año dos mil nueve nosotros

con ezker batua y aralar para

la aplicación de una política fiscal más justa y progresiva basada en el principio tributario básico de capacidad económica que exige que quien más tiene más debe contribuir con el fin de ir incrementando por un lado el nivel y la calidad de los servicios públicos propios de una sociedad avanzada y por otro el gasto social e ir dando cobertura suficiente a las necesidades de prestaciones

por los colectivos más desfavorecidos esto decía la enmienda transaccional que firmamos nosotros en diciembre del año dos mil nueve donde también

en marcha un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal en fin han pasado cuatro años desde entonces fíjense ustedes en aquel debate en diciembre del año dos mil nueve

socialista señor maneiro queda muy bien eso de decir que se incrementen los impuestos a quien más gana y eso señoría es una sublimación de lo obvio si tenemos en cuenta que en todos los sistemas tributarios modernos la progresividad y la equidad forman parte consustancial del sistema

la apuesta en marcha de un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal cuando le recordábamos que se podía hacer mucho más para luchar contra el fraude decía la señora madrigal

creo además que tenemos un compromiso de lucha contra el fraude por lo que tenemos más bien que felicitarnos en fin obviamente no hemos iniciado

que ya por el año dos mil nueve algunos pedíamos cambios fiscales y en concreto una fiscalidad más justa y más progresiva para mantener sostener

a los ciudadanos que peor ya lo estaban pasando en aquella situación de hecho en nuestras enmiendas de totalidad a los últimos presupuestos vascos de estos últimos presupuestos sino también de los anteriores siempre se incluía por parte de upyd la solicitud y la exigencia de una reforma fiscal y la no

año tras año para sustentar y argumentar de totalidad por lo tanto hemos venido pidiendo durante cuatro años una reforma fiscal ahí están los datos no hemos parado de reclamar una reforma fiscal para el conjunto de euskadi y de plantear medidas ahí están los hechos y el partido nacionalista vasco siempre ha estado en contra en contra de impulsar una reforma fiscal y en contra de luchar más y mejor contra el fraude y en concreto ha estado siempre en contra de impulsar

de lucha contra el fraude fiscal cierto es que no solo el partido nacionalista vasco pero el partido nacionalista vasco durante estos cuatro años ha dicho que no no a la reforma fiscal para lograr mayores ingresos y poder sostener las políticas sociales y no a luchar más y mejor contra el fraude fiscal

y más progresiva que siguiera el principio máximo de que quien más tiene más debe pagar que supusiera una distribución más justa de las cargas y que sirviera para sustentar el estado del bienestar las políticas sociales y el impulso a la actividad económica y que evitara recortes sociales

durante los últimos cuatro años como consecuencia de que no se ha querido impulsar una reforma fiscal y no se ha querido hacer más para luchar contra el fraude

una reforma fiscal que sirviera para obtener más recursos públicos pero también una reforma fiscal que incluyera o que fuera de la mano con una reducción del gasto incluyendo la racionalización del entramado institucional

del sector público societario por qué pues porque se trata de destinar los recursos públicos los impuestos a lo verdaderamente importante en lugar de destinarlos a mantener organismos inútiles o una estructura institucional sobredimensionada deberíamos dedicarlos a mantener y mejorar el estado del bienestar la educación la sanidad

y a impulsar la economía productiva y la creación de empleo estable y de calidad y desde luego ahí están también nuestras iniciativas priorizando

upyd se ha caracterizado estos años por defender continuamente en marcha de un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal se nos decía por parte del partido nacionalista vasco que no era en absoluto necesario esta es la realidad siempre hemos defendido una política fiscal basada en los principios de progresividad

y solidaridad y desde luego como ustedes perfectamente saben hemos venido reclamando una reforma profunda del entramado institucional vasco hemos repetido lo repetiremos otra vez hoy aquí que es

de apenas dos millónes de habitantes tenga cuatro parlamentos tres haciendas forales tres políticas fiscales al margen del control del parlamento vasco

solo nosotros lo hemos dicho tan claro ciertamente creo sinceramente que este debate se va abriendo carece de sentido que existan en euskadi tres políticas fiscales diferentes es absurdo que un ciudadano vasco

en función del territorio histórico donde resida no tiene sentido que no hagamos nada para corregir un sistema que permite y fomenta la descoordinación y por lo tanto la desigualdad nosotros por lo tanto volvemos a defender que las competencias fiscales residan en este parlamento sin menoscabo de que efectivamente en nuestro caso consideremos que debamos avanzar una sola política fiscal no ya en españa sino en el conjunto de europa el hecho de que existan tres políticas fiscales diferentes no solo rompe la igualdad

alcanzar la mejor política fiscal posible porque es habitual que ocurra y así ha ocurrido históricamente que cada territorio histórico utilice su política fiscal

ha impedido que podamos tener la mejor política fiscal además euskadi se rige por el sistema de concierto económico pagamos al estado el cupo por los servicios que el estado presta en nuestra comunidad autónoma

sobre esta cuestión pero únicamente diré que es un sistema que

cuestionado por tanto tenemos un sistema opaco confuso caro poco transparente ineficaz e ineficiente que provoca disfunciones y duplicidades y que evita insisto que tengamos la mejor política fiscal posible

del parlamento vasco y defendemos que vayamos cuanto antes hacía una sola política fiscal en el conjunto de euskadi de españa y de europa nos parece indispensable

radicalmente este sistema impulsando todas las modificaciones legales que sean necesarias para garantizar la mayor igualdad ciudadana la mayor igualdad fiscal en nuestra opinión hay que hacerlo

con todo el consenso que ustedes quieran pero en todo caso hay que hacerlo y mientras padecemos el modelo foral y mientras

y mientras padecemos este entramado que no tiene ningún sentido qué es lo que toca hacer evidentemente plantear las reformas fiscales que nosotros consideremos necesarias allí donde puedan

efecto y hemos defendido propuestas y modificaciones concretas para ir hacía un sistema fiscal más justo y más progresivo desde en fin

allí por el año dos mil nueve ustedes siempre se oponían

hemos venido planteando en relación al impuesto sobre sociedades y en el ámbito de las deducciones por incentivos

entre otras proponemos un recorte en la deducibilidad de gastos susceptibles a un uso privado defendemos una reforma y hemos defendido una reforma tributaria que logre una redistribución de la carga fiscal desde las rentas del trabajo hacía las rentas

del trabajo lo hemos venido defendiendo insistentemente defendemos un sistema de sociedades armonizado en el conjunto de españa hemos rechazado y rechazamos

el trato privilegiado que han tenido distintos deportistas profesionales durante largos años lo hemos venido diciendo lo hemos venido planteando en esta cámara

la supresión total del régimen de sociedades de promoción de empresas ustedes se negaban también a ello daban largas decían que no era necesario lo hemos venido planteando en fin infinidad de asuntos defendidos durante todos estos años

el voto en contra prácticamente siempre del partido nacionalista vasco no solamente del partido nacionalista vasco pero principalmente del partido nacionalista vasco ese inmovilismo para dejar las cosas como están para no tocar la fiscalidad y para mantener el privilegio

señora gorospe esto nos ha costado muy caro durante largos años ustedes han boicoteado cualquier tipo de reforma fiscal que tuviera como objetivo tener un sistema fiscal más justo más progresivo y ustedes se han venido negando a impulsar la lucha contra el fraude fiscal y eso es responsabilidad también suya

los que estamos en este parlamento desde el año dos mil nueve lo hemos visto perfectamente que esto ha sido así

a luchar más y mejor contra el fraude fiscal y a impulsar una reforma fiscal ustedes se han venido negando hasta que las circunstancias

o han hecho que ustedes hayan cedido en algunas cuestiones y que fíjense ustedes por donde

recojan fíjense ustedes un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal la puesta en marcha de un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal cuando lo veníamos pidiendo

que pondrá en marcha ese plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal ejemplos todos lo hemos visto ustedes no han querido han dado un portazo a los ciudadanos vascos y como consecuencia de ese portazo y de esos portazos

nos han faltado recursos públicos para impulsar las políticas necesarias

nosotros las hemos defendido las seguimos defendiendo y efectivamente luego las presentaremos en forma de propuestas

con el grupo socialista con el partido socialista yo no sé el alcance que tiene este pacto fiscal yo no sé si este pacto fiscal se va a aplicar o no se va a aplicar yo no sé si se va a aplicar tal como está o de forma diferente dónde se va a aplicar en qué territorio histórico se va a aplicar ni cómo ni cuándo ni dónde ni con el apoyo de quién no sabemos esa es la realidad no lo sabemos por lo tanto nosotros a este pleno venimos con nuestras propias propuestas de resolución que efectivamente algunas en algún caso son novedosas pero que en otros casos

lo que hemos venido defendiendo durante todos estos años mantenemos por lo tanto la coherencia y una novedad por ejemplo el establecimiento de un recargo del tres por ciento

aplicable a las entidades financieras para que aporten también

miles de ciudadanos ya digo más de cincuenta propuestas de resolución vamos a presentar

con cuáles están ustedes de acuerdo y qué es lo que dice esta cámara aunque ya digo e insisto que no sabemos la repercusión que esto puede tener porque las competencias fiscales no residen desgraciadamente en este parlamento conseguiremos que residan finalmente en este parlamento pero a día de hoy no

para hacerlo más razonable y transparente el traslado de las competencias fiscales al parlamento vasco una lucha prioritaria y mucho más intensa contra el fraude fiscal

que garantice las políticas sociales y el estado del bienestar y que impida más recortes sociales creo que mención especial

merecen las propuestas que nosotros hemos venido defendiendo para luchar más

contra el fraude fiscal lo he dicho ya la puesta en marcha de un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal que durante todos estos años ha sido imposible poner en marcha

boicoteadora del partido nacionalista vasco y de algunos diputados generales que querían defender sus propias competencias en lugar de defender el interés general del conjunto de los ciudadanos hoy nuevamente reivindicamos

de lucha contra el fraude fiscal que refuerce y mejore los mecanismos de colaboración coordinación e intercambio de información entre todas las administraciones tributarias que incremente el número de inspectores y el número de inspecciones fiscales ustedes

durante largos años el impulso de la formación continua de los inspectores y de los

la utilización de todos los mecanismos de interconexión de datos que sean necesarios para combatir el fraude fiscal de todos aquellos que sean necesarios solamente los que sean necesarios sí pero todos aquellos mecanismos de interconexión que sean necesarios

por qué estas medidas que hemos venido defendiendo aquí durante largos años por qué no se han puesto en marcha por qué se nos ha dicho permanentemente que no por qué ese boicot cuando eran propuestas perfectamente razonadas y razonables que además provenían muchas de ellas de técnicos ni siquiera de políticos que observaban cuáles eran las necesidades evidentes para luchar mejor contra el fraude por qué o la modificación de toda aquella normativa tributaria que posibilite el mantenimiento de regímenes especiales poco transparentes

y de los plazos de prescripción o la realización de campañas que promuevan la responsabilidad ciudadana o el establecimiento y celebración de reuniones periódicas de todas las administraciones o la ampliación del plazo de prescripción

competencia nuestra vamos a plantear también en una propuesta de resolución que hagamos todo lo posible para suprimir

de las actuaciones inspectoras esto nadie lo ha planteado hasta ahora nadie lo ha dicho en este parlamento y es un tema muy serio y muy grave

en la finalización de las actuaciones inspectoras es decir cuando el político de turno va al inspector fiscal correspondiente y le manda cancelar

hay que hacer que esto no pueda seguir ocurriendo la supresión de las propuestas previas de tributación

la responsabilidad también algo novedoso en el pago de la deuda de las asesorías fiscales en los diseños de ingeniería fiscal

eludir o evitar el pago de impuestos se pueden hacer

muchas cosas muchas propuestas no hacía falta ser un lince hace cuatro años para ver que el sistema tributario vasco era muy mejorable no hacía falta ser un lince hemos venido proponiendo estas propuestas para tener una fiscalidad más justa

y para luchar más y mejor contra el fraude siempre el no por respuesta al decir que este parlamento no podía decir nada y mientras tanto en fin pues

a implementar estas políticas absolutamente justas y absolutamente necesarias me centro en estos últimos minutos en lo que viene a ser

debo decir en primer lugar que no sabemos como decía antes si las medidas contenidas en este pacto fiscal

cuándo se van a aplicar si se van a aplicar estas u otras parecidas si se van a aplicar en un territorio histórico en dos o en tres no sabemos y no sabemos esto como consecuencia de que las competencias fiscales

que la negociación en relación a este asunto la relación la negociación entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi se ha producido fuera de este parlamento porque sabe que

desgraciadamente no tiene las competencias fiscales por eso ustedes han negociado fuera de este parlamento y algo muy importante que además lo saben todos los parlamentarios

y es que han estado negociando

han tenido en cuenta en la negociación cuáles son las mayorías por eso hay algunos foralistas recalcitrantes que se sienten fuertes en esa posición porque saben que condicionan la negociación por eso digo que respecto a este pacto fiscal

cuándo cómo dónde y cuánto de esto se va a aplicar en todo caso

nosotros no tenemos ningún problema señora gorospe en decir que

incluye algunas medidas positivas no tenemos ningún problema señora gorospe porque evidentemente algunas propuestas las hemos defendido nosotros y no somos tan ingenuos

sectarios de oponernos algo que nosotros hemos venido defendiendo por lo tanto sí señor lópez señora gorospe

este pacto incluye algunas medidas positivas pero en nuestra opinión

fallida y una oportunidad perdida porque no avanza suficientemente en la progresividad fiscal y ahí podríamos hablar del tratamiento que se realiza

podríamos hablar de la tarifa general podríamos hablar de la tarifa del ahorro podríamos hablar de la deducción por edad no se incluye una mayor progresividad que

necesaria en nuestra opinión y porque no es acompañada de la necesaria reducción de gasto improductivo superfluo e innecesario y cuando

subir determinados impuestos aunque sea principalmente a una parte de la sociedad lo mínimo que tiene que haber es un compromiso al menos tan claro como ese para reducir gasto superfluo que proviene del entramado institucional o del sector público societario y ese compromiso

no lo vemos es decir nos parece muy injusto que se diga a los ciudadanos vamos a subir determinados impuestos o no nos parece o al menos nos parece que es perfectamente mejorable y sin embargo la reducción del gasto superfluo que a día de hoy sigue existiendo no se produce en absoluto y por lo tanto

y una oportunidad perdida no avanza suficientemente en la progresividad fiscal y no está acompañada de la necesaria reducción de gasto improductivo superfluo e innecesario y en cuanto a que deja el modelo foral que padecemos como está

es un fraude y usted lo ha querido explicar al comienzo de su intervención y ha venido a decir conste que el modelo se mantiene igual que las competencias fiscales residen en las juntas generales y que este parlamento no tiene ninguna competencia entonces qué es lo que estamos debatiendo hoy aquí pues yo creo que esto es un

un error creo que es absolutamente fundamental corregir foral el entramado que padecemos y que las competencias fiscales pasen de las juntas generales al parlamento vasco nosotros vamos a proponer con las propuestas de resolución y veremos por la vía de los hechos quiénes son los partidos políticos que defienden esta propuesta de trasladar las competencias fiscales

y cuáles no para garantizar la mejor fiscalidad posible como decía al principio para acabar con los enfrentamientos territoriales que estos últimos días

a ver todos los días para acabar con los enfrentamientos territoriales para luchar más y mejor contra el fraude fiscal para garantizar la mayor igualdad ciudadana y para garantizar que no haya descoordinación fiscal porque con su propuesta

descoordinación fiscal va a seguir habiendo desigualdad y no vamos a poder tener la mejor política fiscal posible en fin

ahí están nuestras propuestas luego podemos quizás entrar en aspectos concretos del pacto fiscal que ustedes

veremos en todo caso cuáles son las propuestas de resolución que ustedes plantean si van a ser concretas si van a ser genéricas si van a ser evanescentes o qué es exactamente lo que van a proponer ya digo incluye algunas medidas positivas y si ustedes las plantean como propuestas de resolución nosotros podríamos votar

a favor de ella ya digo falla la progresividad se puede hacer mucho más

luchar más y mejor contra el fraude fiscal nosotros vamos a proponer otra vez una considerable batería de propuestas al respecto se puede introducir progresividad en la deducción por vivienda habitual y se puede introducir también progresividad en la deducción por edad además de algunas otras cuestiones

señalaré en todo caso esta es nuestra propuesta

y después finalmente presentaremos una batería de propuestas de resolución

las propuestas fiscales que upyd defiende los postulados políticos de upyd en relación a la fiscalidad no pretendemos también es cierto que sea upyd con un solo parlamentario quien defina el sistema tributario vasco

vamos a plantear una serie de propuestas de resolución y a ver qué es lo que ustedes son capaces de votar y en función de las propuestas de resolución que ustedes propongan si son concretas si no son concretas podríamos votar algunas de ellas aunque insisto el pacto fiscal que ustedes han firmado falla por la base falla en el sentido de que mantiene las competencias fiscales en las juntas generales de los territorios históricos y espero que esto cambie cambie cuanto antes y nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano
cambie cuanto antes y sea aquí donde se debata pero no solamente se debata sino que además se decida la fiscalidad de los ciudadanos vascos gracias eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta señor pastor iniciaba su intervención con una pregunta

después de no discutir durante tantos años en este parlamento de temas fiscales

incluso todos los jueves y todos los viernes en los últimos quince meses entonces el señor pastor nos preguntaba por qué estábamos aquí

con menos floritura que usted estamos aquí porque el partido socialista le ha exigido al lehendakari que tengamos este pleno para que ustedes le aprueben los presupuestos

porque es parte del pacto que han firmado ustedes esto no es un pleno de fiscalidad aquí no venimos

ni vamos a aprobar ningún impuesto aquí estamos asistiendo a la siguiente fase de lo que pactaron ustedes de cómo había que visualizar el pacto al que habían llegado

cumple escrupulosamente y religiosamente el acuerdo que tienen ustedes por eso estamos aquí hoy ya sabemos que da igual lo que se apruebe luego

señor pastor si sus medidas fiscales son tan buenas y tan importantes

hace un mes en las juntas generales para que pudieran estar operativas cuanto antes

octubre no se van a poder presentar sus propuestas fiscales en ningún sitio porque ustedes han preferido retrasarlo porque sus tiempos políticos qué es en lo que estamos le requerían esta foto en este pleno por eso estamos aquí hoy señor pastor yo

no nos venga aquí ahora a decirnos que es que este pacto fiscal que ustedes han firmado es maravilloso y soluciona nada

de traer o de firmar un pacto que está vigente en gipuzkoa desde hace un año qué ha solucionado

pero salvo que en dos apartados que hasta coincide el tipo

los tramos no coinciden pero el tipo sí todo lo demás está vigente hoy en gipuzkoa rige hoy en gipuzkoa sin embargo esto que ustedes nos trasladan hoy que es

tendrá efectos dentro de dos años cuando usted nos dice

se está metiendo miedo a la gente se está diciendo tal se habla de subidas de impuestos oiga es que es una subida de impuestos

en qué apartado de su pacto se le baja los impuestos a alguien en cuál en ninguno en todos sube usted dice no pero los más ricos van a pagar más nosotros nos hemos molestado en hacer el cálculo en álava

del irpf que ustedes dicen van a suponer en álava una mayor recaudación de un millón de euros por tres años tres millónes millónes de euros yo no creo que en gipuzkoa y en bizkaia

tan superior a álava y si hago la extrapolación

en gipuzkoa serán dos y en bizkaia serán seis por tres años dieciocho millónes

pues de esos ricos dieciocho el resto de quién va a salir de quién va a salir si es que se cumple

pero por lo menos se trata de no engañar nos dice usted que esto es para evitar recortes

le recortemos a los ciudadanos sus ingresos y su disponibilidad y cuando digo los ciudadanos digo a todos los ciudadanos

porque ustedes suben hasta el impuesto de transmisiones patrimoniales evidentemente genérico y sin progresividad para todos pero bueno también lo hizo bildu en gipuzkoa el año pasado

esto de subir los impuestos linealmente a todo el mundo nos dice usted que hay modelos y efectivamente hay modelos

y hay por lo menos dos modelos uno es el de acuerdos de políticos para políticos y para que los políticos puedan disponer de más dinero para manejarse ellos

y otro que piensa que en fin que los políticos estamos para que los ciudadanos vivan mejor

y que los ciudadanos creen empleo porque son los que lo emplean y hay otros que piensan que no que la política fiscal como se nos han explicado hoy no está para eso y hay unos que creemos que la política fiscal debe incentivar a las empresas y a los empresarios y a los autónomos a crear empleo

pues bueno pues efectivamente hay dos modelos probablemente habrá alguno más yo en cuanto al fraude voy a ser muy breve y por recordarle al señor pastor y al señor maneiro que en ese acuerdo que ustedes plantean

oiga están en vigor todas en álava en vigor rigen ya y las propuestas del señor maneiro en españa en el congreso de los diputados aprobadas y que las penas sean mayores ya está

a ver si se enteran de lo que está rigiendo hoy para venir a hablar de novedades y propuestas

sí lo somos y no somos nacionalistas otra cosa es que usted cada día se vaya volviendo más pero ese no es nuestro problema el señor pastor nos dice es que aquí se habla de subir impuestos unos hablan de subir y de bajar

o suben o bajan y en el caso de la propuesta que ustedes hacen suben todos y para todos y esa no es nuestra propuesta

va a haber las reformas fiscales en qué dirección van a ir y yo les tengo que preguntar

que la fiscalidad es para hacer política política que acompaña el crecimiento política para crear empleo entonces me quieren ustedes explicar cómo se compatibiliza una subida de impuestos promoción de empleo cero con

no gracias a las medidas de este gobierno sino a las que todos ustedes votan en contra todos los días en madrid a las de mariano rajoy que efectivamente nos va a sacar de la crisis

unas medidas que van a entrar en vigor dentro de dos años teóricamente en contra del ciclo económico en el que estaremos

o perjudican a que se cree más empleo y crezcamos más porque esa es en la situación que estamos la propuesta fiscal que se haga hoy

mañana en las juntas generales va a tener los efectos cuando los va a tener y esos efectos van a ser buenos o malos pero van a ser buenos o malos para el empleo porque la recaudación no se ha caído porque se han bajado los impuestos que han subido todos los años es que igual hay que recordarles a ustedes que es que el paro sigue subiendo

cada vez se cierran más empresas cada vez se recauda menos por impuesto de sociedades de esas empresas que crean empleo no de las otras que no crean empleo de esas

ese es el problema de la caída de la recaudación y dónde está aquí el ajuste del gobierno para adecuar sus gastos a sus ingresos que no está por ningún sitio yo creo que esta administración es un sector cuando menos peculiar

no conocemos ningún sector yo por lo menos no conozco ningún sector en el que en los últimos veinte años haya invertido por ejemplo en modernización y en informática pues probablemente diez mil millónes de euros más o menos llevaremos gastados

del mantenimiento de las propias inversiones en informática cuando una empresa invierte tanto dinero en algo mejoran cosas

modificar sus trabajos se requiere gente más cualificada

en el gobierno vasco incluso cuando una empresa se queda sin objeto social se cambia el objeto social de la empresa pública

para que siga haciendo estas cosas y así llevamos más de veinte años nos decía el señor pastor que el problema de la vivienda no es si hay una deducción o no y nos decía que la deducción de vivienda estaba planteada en su día para favorecer

la deducción en vivienda evidentemente incentivaba un sector de la economía como hay otros que incentivan a otros

pero la primera finalidad era favorecer el acceso a la vivienda

a unas viviendas muy caras ahora que nos quieren ustedes vender que van a bajar la deducción

y adquisición de vivienda para fastidiar a los constructores o sea eso es lo que nos intenta trasladar usted hoy aquí

que lo que ustedes proponen le va a suponer de pagar más cuando le toque dentro de dos años seiscientos euros pero bueno

yo no sé qué entiende usted que rebajar la deducción de los jóvenes por el alquiler de la vivienda

a los jóvenes y a las familias numerosas que es su propuesta pero deben ser que son todos los ricos de este país los jóvenes y las familias numerosas los más ricos de este país

señora gorospe nos dice usted que el acuerdo requiere dejarse algún pelo en la gatera

hasta el mes de julio y recuerdo algunas líneas rojas

son líneas rojas esto no lo vamos a traspasar nunca en el ahorro cómo vamos a poner un tipo en el ahorro mayor que el que pagan las pymes que barbaridad pero aquí está aquí

dejarse pelos en la gatera y otra quedarse sin pelo

es lo que estamos este pleno no sé si es el último pelo del acuerdo que han hecho ustedes

qué quiere que le diga nos ha dicho usted

que el parlamento tiene que armonizar bueno me quiere usted explicar por qué su propuesta es armonizar

con la normativa vigente hoy en gipuzkoa

por qué eso está fuera de su acuerdo por qué lo han dejado fuera porque era muy malo

que a los autónomos les obliga a meter como activos del patrimonio los propios activos del negocio y eso perjudica a las empresas a los autónomos el empleo y todo

y ahora que nos viene a decir que esto es lo bueno en fin nos dice usted

mire nosotros le habíamos oído aquí hablar al señor egiguren en su momento de la flexibilidad socialista que esta era de pues hoy voto que sí y mañana voto que no porque los socialistas como nos dijo él en esta tribuna eran flexibles hoy hemos

al partido nacionalista vasco que es que se mueven unos son flexibles

se mueven pero hacia allí entonces claro

unos antes votaban que no y ahora votan que sí a lo mismo las palabras

las que queramos pero claro no nos vengan aquí a engañarnos diciendo además apelando a la urgencia de esta reforma esta reforma era urgente era urgente en julio

que en julio estuviera ya cerrado el acuerdo fiscal para que las diputaciones pudieran presentarlo y ustedes y nosotros éramos conscientes que con dos partidos no valía y que había que incluir uno tercero y por eso no se ha cerrado muchas cosas

ahora qué pasa que hay que trasladar las propuestas fiscales de bildu a álava y bizkaia donde se votaron en contra

pero no hay que molestar mucho a bildu y entonces no hay que tocar el impuesto de patrimonio porque claro por qué se queda fuera patrimonio le reitero la pregunta y segundo esta propuesta la van a llevar ustedes a gipuzkoa si ya rige qué van a hacer exactamente cómo lo van me gustaría

porque qué van a decir van a plantear la modificación de los tramos del ahorro

y van a plantear la modificación en el impuesto de sucesiones de las cantidades exentas esa es su propuesta fiscal en gipuzkoa hoy

luego nos dicen y nos tenemos que sumar todos a esto porque es que es bueno sumarse porque sí

reconozco la flexibilidad del partido socialista hace muchos años yo les

en el mismo pleno el mismo mes sí no y abstención en los tres sitios en los tres territorios pues esa flexibilidad la conozco hace mucho tiempo la del partido nacionalista la movilidad del partido nacionalista la empezamos a descubrir ahora

y voto no y hoy voto sí pero claro nosotros

nos cuesta más debe ser por esto de que somos foralistas recalcitrantes entonces ahí renqueamos en esto de la flexibilidad y el movimiento

a veces no lo conseguimos pero intentamos ser un poco coherentes entonces es complicado que alguien nos pida que digamos que son fantásticas unas normas

hace unos meses porque considerábamos que eran malas es que el que algo que considerábamos que era malo hace unos meses de la noche a la mañana no nos parece que sea fantástico entonces tenemos ese problema y no entiendo por qué se dice que se asusta la gente decir que se suben impuestos en esta vida si ustedes consideran que es bueno subir los impuestos

mariano rajoy aunque no quería los tuvo que subir y lo dijo y en cuanto pueda los bajará pero ustedes no disimulen no no es una subida de impuestos cómo que no es una subida de impuesto pero no sean cobardes digan las cosas como son digan lo que han pactado

y más a los que siempre pagan a las clases medias que es donde se recauda siempre

cuando le dije a un compañero suyo que se sienta ahí

y su respuesta fue alguien tiene que pagar claro los de siempre

que eso es ser progresista en este país que paguen siempre más los de siempre y la filfa esta del que los que más ganan vamos a recaudar mucho en álava sale uno millón de euros

en otros sitios las políticas fiscales o tienen un fin o no tienen un fin

del pnv en el parlamento vasco ese es el fin

no es un acuerdo fiscal para fomentar el crecimiento económico que las empresas puedan crear más empleo no es para eso

es para lo que estamos en este pleno que se visualice el acuerdo y que se visualice que el lehendakari va a tener votos suficientes para aprobar el presupuesto lo cual es bueno

lo que no tiene sentido es que la excusa que se busque perjudique a los vascos

no porque aquí había que traer al lehendakari y al pnv

hace un año no aquí en las juntas generales y estamos asistiendo a un pleno de políticos para políticos en el que no se va a aprobar nada ni útil ni inútil para los ciudadanos pero que oculta

que al final perjudica a los ciudadanos y que no nos va a ayudar a salir de la crisis en nada ni una sola medida nosotros

al partido nacionalista vasco y al partido socialista del que como siempre que les hemos hecho traslado de alguna propuesta fiscal seguiremos esperando su respuesta

nos pasó cuando estaban ustedes en el gobierno vasco que les dijimos que sí cuando el señor lehendakari nos decía reforma fiscal sí vamos a sentarnos os mandaremos el documento

y hoy seguimos en las mismas nosotros como hemos dicho estamos dispuestos a llegar a acuerdos llegar a acuerdos

no significa quedarte calvo y desde luego nosotros no nos vamos a quedar calvos con este acuerdo

asegurar que evidentemente la política fiscal es muy importante es muy importante en todos los países

la política fiscal dice qué países se fomenta la creación de empleo y qué países

si un país un gobierno está dispuesto a que sus ciudadanos sean libres porque tienen suficientes ingresos o no o prefiere que estén subvencionados

claro que no son iguales los modelos sociales y de política fiscal y esto de las diferencias técnicas que son salvables por unos y por otros

es posible que también y para otros lo que algunos consideran diferencias técnicas nosotros no las consideramos que son

voy a recordar solo dos cosas todas las propuestas que nosotros propusimos en su momento eran tendentes a favorecer

en un momento que lo tienen difícil para acceder a los créditos y lo siguen teniendo difícil y lo van a seguir teniendo difícil y a la creación de empleo al mantenimiento y a la creación de empleo y otras medidas eran

ayudarles fiscalmente lo que nos encontramos va en la dirección contraria perjudica fiscalmente a todas las familias

y el incentivo a la creación de empleo y a la economía brilla por su ausencia

si todas las propuestas que nosotros tenemos en materia de incentivos a las empresas

la de incentivo a la economía y el bienestar de las familias

porque políticamente interesa para perjudicar a la gente no estamos

otros que hagan lo que quieran y por lo tanto nosotros seguiremos dispuestos a arreglar el desaguisado que han pactado ustedes

pero que nosotros estemos dispuestos a arreglar ese desaguisado no significa que ustedes lo estén porque tampoco somos tan tontos

cuando se intenta trasladar a álava y a bizkaia lo que está rigiendo hoy en gipuzkoa

por lo tanto ya están ustedes tres ya están tres

tendrán que hacer una propuesta que sea mucho más progresista que la que tienen vigente hoy en gipuzkoa para desmarcarse de esto pero claro es que las cosas

son como son si yo miro el irpf y la modificación que hacen en la tarifa es que ni siquiera

las bases los tramos si miro la del ahorro salvo los tramos los tipos son iguales las rentas irregulares iguales indemnización por despido iguales deducción por compra de vivienda aportaciones al sistema de previsión social

yo creo que con esto que vamos a hacer le vamos a dar los ricos de este país se van a enterar porque estos son los que están

a los sistemas de previsión complementario de pensiones todos los días porque están preocupadísimos los ricos de este país con la pensión que van a cobrar

para gente como el señor botín esto no es un palo para los funcionarios

esos no van a pagar más impuestos con esto que ustedes proponen

los trabajadores especialmente en gipuzkoa que es donde más hay

no creo que los banqueros estén especialmente preocupados por esta reforma fiscal que ustedes plantean que ustedes proponen

si es una de las reformas estrella subir el impuesto de transmisiones patrimoniales a todo el mundo a todo el mundo

la progresividad y la equidad de esta propuesta no sé dónde está exactamente pero bueno esto es lo que ustedes plantean y esto supone de entrada encarecer

la adquisición de la vivienda que si le sumamos lo que quitamos de la desgravación significa que encarecemos la vivienda

los vascos a los bancos para poder acceder

por el mismo precio y eso señor pastor es subir impuestos y eso señor pastor no es subir impuestos al que gana más de noventa mil euros

los que pagan de los que se recauda y yo por tanto voy a terminar porque se me está acabando el tiempo para decirles que nuestra propuesta fiscal que la conocen todos que además como nos parece que es importante

que decía el partido nacionalista vasco de aprobar esa reforma fiscal para crear empleo y crear las condiciones necesarias para que las empresas puedan crear más empleo nosotros la hemos llevado al sitio competente donde se pueden aprobar y donde se tienen que aprobar las reformas fiscales que es a las juntas generales de álava claro

y sí es importante y como son medidas buenas que favorecen la creación de empleo queremos que se aprueben cuanto antes

y por eso están tramitándose ya en álava no estamos aquí

si el pacto fiscal rige en gipuzkoa en álava en las juntas están tramitando ya la reforma

por qué estamos aquí hablando de fiscalidad cuando es mentira eskerrik asko

la necesidad de modificar la política fiscal que ellos mismos han desarrollado en las últimas décadas pero en el fondo no deja de ser más que una mera declaración

con el apoyo de los socialistas en muchos casos ha estado orientada a conceder privilegios a las rentas de capital y a disminuir la presión fiscal sobrelos beneficios de las empresas

ello ha supuesto mermar la capacidad recaudatoria del sistema tributario con la propuesta que se nos pone sobre la mesa

que hacer afirmaciones de este tipo es demagogia no sé si ha cambiado de parecer el señor urkullu lo que sí le quiero decir con absoluta claridad es que para eh bildu no es demagogia es más eso mismo lo que está intentando hacer en las instituciones que gobierna eh bildu como la diputación de gipuzkoa o también en más de cien municipios lo que es demagogia es decir

y que por tanto además se convierte en falso en papel mojado a la ciudadanía hay que hablarle claro

que apostar por la justicia social la igualdad la progresividad y la equidad no es demagogia

estamos empeñados en avanzar en la consecución de ese objetivo eta herritarrei

horrek erakusten digu adibide xume bat da muga horiek adierazteko somos conscientes que hoy por hoy no tenemos los instrumentos para decidir la gran mayoría de las políticas

coincidiremos al menos en que no tenemos soberanía por ello entendemos que ese es el acuerdo de país que necesita euskal herria recorrer conjuntamente la vía vasca que tenga como meta obtener todas las herramientas que nos permitan dar una salida social a esta crisis sistémica no este acuerdo que responde más a necesidades propias